la calidad y seguridad alimentaria de la anchoa del cantábrico

a una alarma social generada por el anuncio del gobierno

isiltasuna mesedez la detección de un alto porcentaje del parásito anisakis en la anchoa del cantábrico

popular entendemos que el gobierno vasco actuó de manera precipitada descoordinada y sin medir las consecuencias el anuncio de trazo grueso sobre la detección de este parásito se convirtió en un dardo envenenado para los consumidores a los que se

y también a parte del sector principalmente establecimientos de venta al por menor y la restauración cuando está en juego la salud de los ciudadanos tenemos

informar pero informar de forma clara transparente con datos sobre cuáles son los riesgos de su consumo pero esto no se hizo así si repasamos brevemente lo ocurrido recordamos cómo el dos de mayo la señora tapia

responsable del área de pesca nos anunciaba el inicio de la campaña de la anchoa y además animaba a los consumidores al consumo de este producto

y además nos hablaba del impacto positivo que su consumo

es promocionar el consumo en fresco de la anchoa y reintroducir

después del parón que habíamos tenido en los años atrás en la captura de la anchoa tal vez esto último sí se ha conseguido tal vez lo que se ha conseguido es que esta campaña más que nunca coincida el rótulo

de la conserva pero señorías a los cinco días de este anuncio el señor consejero

anunció desde el departamento de salud que se había detectado un alto porcentaje del parásito anisakis en la captura de la anchoa del cantábrico recomendando no comer anchoa en fresco además de unos consejos de manipulación y consumo todo esto

dato comparado ninguna cifra solo se hablaba de un alto porcentaje hoy

sí sabemos los datos comparados y tal vez no había que haber esperado al siete de mayo de dos mil catorce para incidir en los riesgos que puede tener

en determinadas variedades de pescado y la evolución

que los controles de la detección de anisakis van teniendo a lo largo de los últimos años

aumentaba de manera pues creo que importante y cómo también el número de afectados en los dos últimos años ha avanzado pero el señor pues en plena campaña de la anchoa salió con este dato que francamente alarmó a la ciudadanía

sin nada nuevo lo que nos venía a decir es que sí se puede comer anchoa que no hay ningún problema total que en quince días señorías

a aconsejar el consumo de la anchoa y como decía

quince días tres semanas lo que apuntaba como una muy buena campaña de la anchoa se convirtió en un mar de dudas para los consumidores que en gran medida optaron por no consumirla

desde el grupo popular tenemos muy claro que el gobierno tiene la obligación de velar por que los alimentos lleguen al consumidor

la salud de los consumidores recientemente elika hacía público el informe anual sobre la seguridad alimentaria en la prensa del país vasco en el año dos mil trece informe realizado en colaboración con la universidad del país vasco

por qué no participa el departamento de salud y kontsumobide en este informe porque también hay un área importante de salud y de consumidores que les afecta directamente

es ayudar a los consumidores y a la sociedad en general a entender los motivos de las decisiones

y además dice que es esencial que tanto las administraciones públicas como las empresas privadas deben ser en seguridad alimentaria transparentes y deben de ofrecer la información de forma clara y completa tal vez

no estaríamos hablando hoy de esta alarma desproporcionada generada a nuestro entender por un anuncio hecho de manera precipitada como decía descoordinada y sin tener en cuenta las consecuencias y en esta línea va la moción que presentamos hoy donde instamos al gobierno vasco a que de manera

una vez más en esta cámara los departamentos de salud desarrollo económico

realicen un protocolo de actuación para la comunicación en casos de riesgos alarmas y alertas alimentarias

que instamos al gobierno a que realice campañas divulgativas de los valores nutricionales de las distintas variedades de pescado que frecuentemente se encuentran en nuestros mercados

y también de la importancia del sector pesquero para la comunidad autónoma vasca y como tercer punto insistíamos en que se cumpla de manera urgente el mandato parlamentario

de esta cámara al gobierno en materia de seguridad alimentaria en octubre de dos mil trece

un borrador de un plan de seguridad alimentaria que contenga análisis de riesgos plan de control de la cadena alimentaria planes de información de investigación y formación en seguridad alimentaria plan de coordinación interinstitucional

cincuenta y seis de la ley de política agraria y alimentaria quiero decir que este mandato ha pasado de tiempo ya

entendemos que ya no será borrador lo que tengan que traer a esta cámara que será un plan de seguridad alimentaria con los contenidos que se le explicaba al gobierno se le explicitaba al gobierno enmienda de transacción aprobada bueno decir que esta moción no ha tenido enmiendas entonces esperaremos a que los grupos se posicionen en su intervención nada más muchas gracias

evidentemente no hemos presentado enmienda y votaremos a favor de la moción planteada por el grupo popular creo que hay asuntos que

centrar en ello en que más allá de las diferencias que puedan haber surgido por esta cuestión creo que principios fundamentales

los compartimos todos por un lado compartimos que la pesca es una actividad tradicional en el país vasco de gran importancia social

la pesca ocupa un lugar de especial relevancia entre los recursos naturales de euskadi poseemos un gran número de especies y ocupamos una posición importante en relación al número de capturas así como al número de pescadores sabemos la importancia que tiene la pesca en relación al pib y en relación al empleo aunque desde luego su importancia digamos que socio económica es mayor que la que puedan reflejar determinados datos sabemos del atractivo

en euskadi y en fin hay una serie de datos que no quiero trasladar por no perder el tiempo pero que inciden en esta cuestión y que todos

de la pesca para euskadi todo esto por lo tanto podemos compartirlo todos los grupos parlamentarios y también podemos compartir y me remito a lo que fue la interpelación del grupo popular que da lugar a esta moción

la parlamentaria del grupo popular y la consejera del gobierno vasco en otra serie de hechos que también se pusieron de manifiesto la importancia de consumir

la importancia de consumir productos cuyo consumo es beneficioso además de por la calidad por los positivos efectos sociales que aporta tanto como para la generación de empleo como para el futuro del sector de la pesca en este caso

ante cualquier situación de peligro para la salud de los ciudadanos y de informar como se ha dicho de una manera que no sea contradictoria precipitada descoordinada o alarmista la importancia de que el gobierno vasco

la salud de los consumidores la importancia que tiene que el gobierno vasco informe de forma clara transparente prudente y completa sobre los riesgos en el consumo de alimentos para que los ciudadanos podamos recibir toda la información que requerimos y recibirla además de modo adecuado la importancia de que el gobierno vasco no confunda a los ciudadanos

ni perjudique el futuro de ningún sector y la importancia

de defender los intereses de los arrantzales de euskadi comprometidos con una pesca responsable y artesanal incluso podríamos estar también de acuerdo en mantener

en este pleno para que podamos escucharnos creo que hasta aquí

básicamente de acuerdo el asunto creo que es la nota de prensa que divulgó el gobierno vasco el pasado día seis de mayo es correcta o es

en que el gobierno trasladó información sensible al conjunto de la ciudadanía fue adecuada o no fue adecuada fue mejorable o no fue mejorable se puede mejorar de cara al futuro

y en este caso es evidente que también se puede mejorar la actuación del gobierno vasco en relación a esta cuestión el gobierno vasco señaló que la nota de prensa con la que da a conocer la aparición del anisakis en la anchoa no fue en absoluto

si observamos la nota de prensa vemos que en esa nota de prensa

se señala que se ha detectado la presencia de anisakis en las capturas de anchoa en un porcentaje muy importante se dice que el anisakis es un parásito relativamente frecuente

de consumo habitual y se recomienda mantener una serie de precauciones para evitar posibles complicaciones y ahí efectivamente se señala cuáles son las posibles precauciones que los consumidores deberíamos se señala también en esa nota de prensa que se va a continuar realizando una vigilancia permanente tanto en los mercados de abastos como en los establecimientos de restauración colectiva y se recuerda que el anisakis es un contaminante natural y habitual

que generalmente se encuentra en las vísceras y que con preparación y un tratamiento culinario adecuado se evita el riesgo

esto es lo que decía la nota de prensa y se termina diciendo que esta situación

para que el consumo de pescado siga formando parte de una dieta equilibrada y variada siempre que se tomen las medidas indicadas es esta nota de prensa

es poco rigurosa fue lo que hizo que bajara el precio de la anchoa

como señalaba la consejera la bajada en el precio duró más bien poco o se mantuvo en el tiempo que baje el precio de la anchoa es suficiente para decir que la nota de prensa fue alarmista poco rigurosa o incorrecta

el gobierno vasco trasladó el gobierno vasco algún dato erróneo incorrecto inconcreto contradictorio o alarmista pues yo ciertamente tengo que decir que tengo muchas dudas

la salud es lo primero por lo que tiene que velar el gobierno vasco en relación

ciertas dudas y no me atrevo a afirmar ni a decir que la decisión la nota de prensa la forma de comunicar del gobierno vasco fuera

decirlo así evidentemente las cosas se pueden hacer mejor y en este caso concreto quizás el gobierno vasco tendría que haber

en las formas y los modos que tenemos los ciudadanos para evitar los riesgos quizás en ello se tenía que haber insistido y quizás no se hizo y quizás el gobierno tendría que haber hecho una labor más intensa pedagógica para trasladar a la ciudadanía esos consejos que por cierto gran parte de la ciudadanía ya los conoce para que no hubiera ningún tipo de problema en relación a la intoxicación con el anisakis quizás esto ciertamente lo que se pudo mejorar pero por lo demás me parece exagerado decir que la forma de comunicar del gobierno o la nota de prensa fuera alarmista fuera contradictoria y que creará alarma social en la ciudadanía todo se puede mejorar pero yo observando los hechos leyendo la nota de prensa y escuchando qué es lo que dijo el gobierno

bastante adecuada más allá de que se pueda mejorar por lo tanto se trata de insistir

saludable que debe estar presente en la dieta al menos dos o tres veces por semana no es razón suficiente para dejar de tomarlo tal como se señala en la web en todo caso se trata de trasladar la información correcta a la ciudadanía

que por cierto sabe mucho más de lo que algunos creen obre

siempre hay margen para informar y comunicar mejor a la ciudadanía pero no me parece que quepa en este caso acusar al gobierno de desinformar a la ciudadanía causar alarma o informar de fecha incoherente y contradictoria

y se mantenga silente obviando la necesidad que tiene de velar por la salud y la seguridad de las personas nosotros pensamos que esto último es algo absolutamente irrenunciable y seguramente el principal objetivo del gobierno es por lo tanto obligación del gobierno velar por la salud y la seguridad

informar a la ciudadanía de todos los riesgos y evidentemente trasladar una información completa por lo tanto en este asunto como en tantos otros

buenos argumentos y sentido común creo que esta debe ser la guía de la actuación del resto de grupos parlamentarios y también la actuación del gobierno en relación a la moción planteada por el grupo popular

con cada uno de los tres puntos el primero de los puntos señala y pide al gobierno que realice un protocolo de actuación para la comunicación en casos de riesgos alarmas y alertas alimentarias yo quiero pensar que el gobierno ya tiene ese protocolo

esta forma de actuación haya que ir mejorándolo pero instar en el año dos mil catorce a un gobierno para que elabore o realice un protocolo de actuación para la comunicación en caso de riesgos

ciertamente excesivo salvo que no exista ese protocolo cosa que dudo

que cumpla de manera urgente el mandato parlamentario del diecisiete de octubre de dos mil trece en materia de seguridad alimentaria que ya se aprobó en esta cámara nada más y muchas gracias

gracias presidenta buenos días el pasado

desde el grupo parlamentario socialista hacíamos una pregunta a la consejera del departamento de desarrollo económico y competitividad requiriéndole si entendía que se había dado una información adecuada

un efecto en la comercialización de la anchoa la consejera nos dijo entonces que la actuación en lo referente a la emisión de la nota informativa había sido perfectamente coordinada medida y bien trabajada entre los departamentos de desarrollo económico y competitividad y el departamento de salud

y cito literalmente se había actuado de forma correcta y responsable y que en su conjunto la campaña de la anchoa no se había visto afectada por la misma

señalaba que una de las responsabilidades del departamento de salud era garantizar la seguridad alimentaria y recordar cuantas veces fuera preciso

sin riesgos sanitarios lo dije entonces y lo mantengo hoy pero lo que hoy nos ocupa tratamos de poner en evidencia dicha nota no por inoportuna sino por no tener y estar fuera de cualquier criterio de comunicación adecuado teniendo un impacto más que notorio porque pocas veces

una información que se divulgó en todo tipo de medios de todas las líneas editoriales de todos los ámbitos geográficos y todas interpretaron igualmente que esa nota informativa del departamento de salud era una alarma sanitaria

el diario montañés abc deia la voz de galicia el diario de navarra la cadena ser

la nota que emitió el departamento de salud el ocho de mayo decía en el marco de las inspecciones habituales realizadas en los alimentos frescos que entran en la cadena alimentaria se ha detectado la presencia de anisakis en las capturas de anchoa en un porcentaje importante y esta afirmación así realizada en un principio y emitida como nota desde el departamento de salud tuvo un eco inmediato en los medios digitales

audiovisuales a toda la prensa escrita de ámbito nacional incluida la económica y provocó incluso la reacción de otros gobiernos de otras comunidades autónomas

en los días siguientes como consumidores que acudíamos a las pescaderías pudimos tener un conocimiento directo de cómo no se vendía

y tuvimos constancia de las quejas de los agentes del sector a través de los medios de comunicación con un eco especial en euskadi

que su alarma había sido eficaz y los socialistas vascos que no entramos a valorar la eficacia desde el punto de vista de la seguridad alimentaria sí queremos poner en evidencia la repercusión que la forma de informar por parte del departamento de salud del gobierno vasco ha tenido en todo el sector de la pesca de la anchoa y en esa campaña de promoción de la anchoa del cantábrico

el propio gobierno vasco una semana antes seis días antes con un producto que se había promocionado con dinero público y que pretendía poner en valor la anchoa del cantábrico y además defender los intereses de los arrantzales vascos

responsable y artesanal y con la primera frase de esa nota informativa considerada como una alarma por todos esta promoción del gobierno vasco al traste por mucho que se nos quiera vender o se nos quisiera vender hace quince días que la acción había sido coordinada entre el departamento de desarrollo económico y competitividad y el departamento de salud hubo un error en la forma de comunicar y no se ha querido ni reconocer ni enmendar por parte del gobierno vasco

se señalaba que la noticia había sido recibida con preocupación por los arrantzales de la flota de bajura quienes temían que la noticia pudiera afectar al consumo decían los arrantzales solo nos faltaba eso el revuelo sobre el anisakis nos va a perjudicar y la cadena ser señalaba que las ventas de anchoa habían descendido

en otros medios de comunicación se decía cae el consumo de anchoa tras alertar el país vasco del anisakis

afecte de manera importante a los consumidores sin embargo por parte de la consejería de desarrollo económico y competitividad se nos respondía con insistencia que tras esa alerta sobre el anisakis las ventas de anchoa ningún impacto porque se había podido modificar el destino del consumo y esta afirmación es el último eufemismo encontrado por el gobierno vasco para reconocer que en las pescaderías

cayeron las ventas es como cuando una ministra española de trabajo en lugar de hablar de emigración por falta de trabajo por falta de empleo habla de movilidad laboral

ese dato estadístico que decía en un porcentaje muy alto

derivó en una alarma innecesaria que alguien alerte por razones estadísticas de mayor presencia de anisakis

a enfermar por anisakis y el pasado doce de junio en una presentación en san sebastián de la primera semana del txakoli la anchoa y el bonito se decía por parte

director a la sazón del departamento de pesca se decía que la campaña de la anchoa había finalizado con un sabor agridulce ya que había sido

en su consumo por la presencia de anisakis de la que alertó el gobierno vasco a su juicio esa pérdida había quedado compensada por mayores compras de las conserveras por tanto lanzar una nota de prensa descubriendo y advirtiendo el consejero en primer término de una estadística y hacer a posteriori las recomendaciones ha concluido en un hecho objetivo que es la generación

y de un desasosiego en los consumidores y en todos los agentes del sector para eso para evitar ese tipo de cuestiones

esas actitudes que nos han llevado a esta complicada situación consideramos necesario realizar un protocolo de actuación para la comunicación en caso de riesgos alarmas

y las recomendaciones para su consumo sin duda fomentarán los esfuerzos de un importante sector como el pesquero en nuestra comunidad autónoma y también estamos de acuerdo como no podía ser de otra manera en requerir al gobierno vasco el cumplimiento del mandato parlamentario en materia de seguridad alimentaria

el diecisiete de octubre del pasado año en el que se planteaba entre otras cuestiones la realización en el plazo de seis meses de un plan de seguridad alimentaria que fuera

las metodologías de actuación en materia de comunicación por tanto

se ha reconocido tarde hubo un error en la forma de comunicar solo que había sido ya demasiado tarde y han tenido que reconocer que ha habido un retraimiento en el consumo y en las ventas de anchoa del cantábrico y esperamos que

no se vuelvan a reproducir hechos como estos muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea eh bildu taldearen ordezkaria den lazarobaster jaunak dauka hitza

es un guión borrador de los contenidos del plan que previsiblemente tendrá el siguiente índice eta ondoren hiru orritan

y que tiene que seguir representando los intereses de todos los vascos baldío

aplíquese ustedes y póngase todas las ikurriñas cuando ustedes aplican las leyes españolas yendo al tema como dijo el tan por tantos admirado obama hoy hay más cosas que nos unen

y eso señora lópez de ocariz gracias a dios ocurre con frecuencia entre nosotros eso lo sabe toda la cámara

como para que parezcan sino acuerdos al menos empatías en realidad en este tema que nos trae

pero casi seguro el origen de las mismas nos separa digamos que hemos llegado a lo mismo desde puntos de partida diferentes y si bien lo relevante es el final es la meta

los hay en más de treinta y cinco especies de peces y su tasa de parasitación depende de edad talla y zona de captura nunca de la frescura del pez

mayor tamaño y más al norte esté este pez mayor parasitación y como casi todos saben la especie más parasitada

un consumo accidental de anisakis puede causar en los humanos

si la primera no es grave aunque es muy molesta la segunda puede llevar a la anafilaxis lo que ya es bastante más serio en euskadi

en los adultos de cuarenta a sesenta años con unos trescientos casos de alergias al año por un lado somos muy consumidores de pescado

y consumimos bastante como fresco o escasamente cocinado acabada la didáctica del anisakis analicemos lo ocurrido el pasado mes de mayo no voy a extenderme mucho porque hace escasamente dos semanas la consejera de desarrollo económico y el consejero de salud le explicaron suficientemente el caso

quienes llevan más de diez años analizando el asunto y evaluando el riesgo tras todo ello los dos departamentos implicados deciden publicar una nota de prensa conjunta para comunicar el asunto a la opinión pública

aguantar la respiración y poner unas velas a algún santo a alguna virgen

a que no estaríamos hoy discutiendo de lo mismo a que hoy estaríamos debatiendo sobre la inoperancia la inacción del gobierno ante un caso de riesgo alimentario es difícil equilibrio

es el difícil equilibrio entre economía y salud se comunicó se recomunicó y aunque surgieron voces críticas porque el mercado de pescado se hundía ninguna catástrofe ocurrió

porque seamos serios señora lópez de ocariz la visita a una pescadería un día incluso toda una semana no supone una estadística lo suficientemente seria

como no es fiable estadísticamente que yo haya visto por primera vez que así ha sido un anisakis en la anchoa al limpiarla eso no indica

la campaña empezó entre el siete y el once de abril con capturas esa semana de ciento treinta mil kilos y un precio de dos coma cincuenta y siete euros

el kilo la semana previa a la nota de prensa entre el veintiocho de abril y cuatro de mayo se pescó entre un millón setecientos diez mil kilos a dos coma diez euros de media

podría parecer una bajada exagerada pero pensando que en economía funciona bastante bien la ecuación entre oferta y demanda hay que recordar que esa misma semana

el precio había bajado un treinta por ciento y las capturas habían subido un cien por ciento

el precio se volvió a poner en dos coma dieciséis euros el mismo o algo superior que la semana previa a la crisis y se pescaron un millón novecientos cincuenta mil kilos en otros números la facturación de aquellas tres semanas fue la siguiente la previa a la crisis tres millónes seiscientos mil euros la de la crisis cuatro millónes ochocientos cincuenta mil euros

desde su propia gestación lo son cada elemento de una nota de prensa tiene un enorme peso cada palabra con la que se transmite esa nota en los medios de comunicación es trascendental

son relevantes lo que no quita que de cuando en vez hay que hacerlo y se hace porque los protocolos de riesgos alimentarios lo prevén si alguien cree que algún consejero busca notoridad se equivoca si alguien sugiere

cuando los servicios de inspección detectan algo cuando los centros especializados contrastan los datos ante un riesgo alimentario real democrático ético y solidario actuar por mucho que alguien se enfade por pensar que se ha expuesto a algún sector económico a la catástrofe que como les he intentado mostrar no es el caso alguien piensa que no se debió comunicar el caso de las vacas locas aun a riesgo de

alguien piensa que no se debió comunicar la crisis de los pepinos ecológicos alemanes aun a riesgo de hundir el mundo pepino hay que ser prudente no hay que precipitarse pero ante una duda razonable la administración debe actuar es preferible eso a riesgo de que critiquen que promocionar los yogures caducados

y luego negar su legalización como negando la existencia de algo que

ha hecho mucho menos daño al sector económico dependiente de la anchoa en su integridad

de su pesquería decretada por el ministerio de agricultura y pesca cuando todavía queda cupo pendiente y días para ejercer su pesquería lo que nunca apoyaremos

que ante una marea roja contaminadora de los mejillones dijo aquello de que hasta que no se llegué al millón de diarreas pues el tema no es preocupante

cuántas anasikosis hubieran hecho falta para declarar el riesgo con cuántas anasikosis hubieran puesto el grito en el cielo por no haber declarado el riesgo

dicho esto que supone que en el origen no mostramos de acuerdo le reitero que en la conclusión vamos a llevarnos estupendo que es lo que a mí más me gusta

no sea que cumplamos lo que nos dijo john lennon de que la vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes respecto a cumplir

cómo no vamos a estar de acuerdo si nosotros lo apoyamos por cierto si no está todo terminado casi seguro es porque aunque prácticamente finalizado

la verdad es que no pensaba intervenir pero llama la atención que desde

quiera tapar con un dedo el sol si todos los medios de comunicación los más afines a el gobierno como los más alejados todos interpretaron igual que era una alarma no es que nos parezca a algunos es así y eso es lo que se trasladó a los consumidores por lo tanto no ha habido una quiebra en el sector pesquero

a las conserveras pero sí para los establecimientos de venta al por menor han tenido

un problema encima del mostrador de estar la anchoa en un lugar preferente a ponerla casi tapada en una esquina para evitar

por lo tanto señor tellería si lo hicieron coordinadamente

y si lo hicieron descoordinadamente también lo hicieron fatal por lo tanto lo que necesitamos es que de una vez por todas

y pesca y alimentación y elika y kontsumobide trabajen conjuntamente y de manera coordinada recientemente hemos visto el informe que le he dicho antes de elika sobre cómo se presentan las alarmas

y los riesgos en la prensa del país vasco y le he dicho lo que dicen elika

ajeno al gobierno que es parte del gobierno de entrada

de entrada no participan por lo tanto coordinación

no existe y lo que dice es que hay que medir porque viendo los resultados que se nos han pasado ahora los casos de anisakis no se dan en la restauración se dan en el domicilio privado por lo tanto a la hora de informar también hay que informar eso y salvamos a la restauración de esa carga que ha tenido que retirar la ancho de sus

por lo tanto se ha dado mal cuál es alto porcentaje como les decíamos

un setenta por ciento no es suficiente para evitar casos de afectados de anisakis no era suficiente por qué no se hizo en el dos mil trece

por qué es que señor tellería vamos a asumir que no se han hecho las cosas bien creo que es mucho más responsable

esta situación porque en los dos últimos años los casos de personas afectadas por anisakis

considerablemente por eso tiene que haber una llamada de atención pero no justo en medio de la campaña de la anchoa sino que durante todo el año porque no solo la anchoa

que también tienen un porcentaje de anisakis y que también puede haber afectados por lo tanto cuando se informa hay que informar de manera transparente y completa no con una línea de trazo grueso

especificar a quién va dirigido esa información y aclarar los términos por lo tanto señor no se hizo correctamente y si hay un protocolo para hacer eso habrá que modificar el protocolo porque está bastante mal

sí gracias presidenta lo que quedaba claro en esta el pasado treinta de mayo era que por una inadecuada forma de dar una información de comunicar una estadística se había comprometido

causando alarma en los consumidores vascos y muchísima inquietud en los agentes del sector además de haber puesto en entredicho por una descoordinación entre consejerías del gobierno vasco la campaña de promoción de la anchoa del cantábrico en euskadi que tiene un coste importante lo vuelvo a recordar para el erario público

decía algún portavoz que había que

no no no no hay que equilibrar el decir o no decir hay que decir solo que no ha sido la forma en el decir la forma de comunicar

lo que el asunto que hoy estamos tratando la complicada situación que se ha vivido durante más de diez días y este debate ha surgido porque las cosas no se han hecho bien por parte del gobierno vasco y porque lejos de reconocer un error el gobierno vasco se empecina en mantenerlo y no se han hecho bien las cosas si tenemos en cuenta que a día de hoy no disponemos tal y como acordamos en octubre

de un plan riguroso de seguridad alimentaria que de haberse dispuesto a tiempo de dicho plan

hablando del tema del anisakis y de la anchoa del cantábrico y a pesar de haber tenido hace unos años en euskadi experiencias de gestión de crisis alimentaria como la de las vacas locas

para preservando la seguridad alimentaria del consumidor proteger también a la vez la producción y al sector ganadero pero lamentablemente en este caso del anisakis de la anchoa del cantábrico no se ha acertado en esa necesaria coordinación

han negado razones de alarma los arrantzales se han quejado los trabajadores y trabajadoras de las pescaderías

durante muchos días y los consumidores nos hemos enfrentado con desconcierto a la compra y al consumo de un producto que nos decían que tenían un importantísimo nivel de anisakis

retraimiento en las ventas retraimiento en el consumo de la anchoa miren nosotros el grupo socialista hacíamos una pregunta hace escasas fechas a la consejera de desarrollo económico y competitividad sobre

repercutido la venta de la anchoa y el tema del anisakis y se nos decía

está dirigida al sector minorista supermercados cadenas de distribución

pero luego recibimos respuestas por parte del gobierno vasco en la que realmente no se sabe cómo ha repercutido o no se nos dice cómo ha repercutido en la venta al comercio minorista pues en fin nos hace dudar de dichos datos no y por lo tanto algún error aunque tarde

y en cambio en otras especies en las que es habitual encontrar anisakis aquí se ha mencionado

y la ciudadanía además sabe cómo proceder para manipular dicho pescado y no tener ningún riesgo sanitario en la alimentación

avanzar en esa necesaria mejora de la seguridad alimentaria de la ciudadanía vasca y que además sepamos o se pueda compatibilizar con la protección de los sectores productivos
alimentarios de eso se trataba en el día de hoy gracias eskerrik asko corcuera andrea

están intentando meter el anisakis y la anchoa en la política y dejen a la biodiversidad en paz están intentando pervertir este debate

los saludos y adoraciones al rey de su representante en madrid señor errekondo

insisto dejen al anisakis y a la anchoa fuera de la política es la biodiversidad unos viven libres y otros parasitan

por cierto señora lópez de ocariz cuando elika hace un informe el informe también lo hacen salud y kontsumobide

es como decir que el gobierno ha emitido un informe

es curioso que haya tenido que recordad el representante de upyd al que agradezco

porque la nota era completa alertaba pero decía cómo se podía zanjar el problema y yo no quiero matar al mensajero pero si todos los titulares de todos los medios sacaban en titulares la alerta y luego en el cuerpo de la noticia hablaban de cómo se zanjaba el tema

pero en el cuerpo de las noticias y si la gente lee el cuerpo de las noticias pues lo sabe no obstante por qué se alertó

en los hospitales el ocho de mayo y el nueve de mayo subió

el diez de mayo bajó en cuanto salió la nota a costa de qué pues seguramente de no consumir

cuando la crisis de las vacas locas durante un tiempo subió enormemente aquel consumo por qué subió el de la merluza que también está afectada por anisakis

y sabe cocinarla pero es que la anchoa ya lo he dicho y lo dijo el consejero de salud particularmente la anchoa se consume en crudo en fresco en gran cantidad

que no se podía consumir porque es cierto que

algo que no se había producido hasta entonces y porque estaban entrando en las urgencias

el ocho de mayo más de dieciséis casos por tanto hubo que actuar es una alarma claro que es una alarma

y a partir de ahí existe un protocolo de riesgos que como todo en esta vida habrá que actualizarlo porque se van ganando experiencia cada vez que se actúa y que hay

pero no le quepa ninguna duda que cuando una nota de alerta alimentaria sale el producto

inmediatamente afectado durante un tiempo hay que intentar paliar pero sobre todo hay que intentar paliar los efectos perniciosos sobre la salud que pudiera producir muchas gracias

originalmente del partido socialista el partido socialista se ha pronunciado en otros ámbitos institucionales a favor de la abolición del irph

y empezaré por la cuestión más importante de lo que ha dicho usted

es verdad que la representación que el partido socialista de euskadi

en una entidad que usted ha señalado no concuerda con el planteamiento que el partido socialista tiene programáticamente y que ha venido a manifestar en aquel entonces y que vuelve a manifestar hoy aquí es decir el que habla en este momento en nombre del partido socialista es este parlamentario no cuenta con esa autorización no obstante debo decirle que

tienen que ver con el hecho de que existe la creencia que seguramente está soportada por la realidad no en el caso del partido socialista

entendiendo que van a desempeñar su tarea conforme a su leal saber y entender el partido socialista no nombra comisarios y esta es la razón de la discrepancia entiendo que en su momento

este asunto tendrá su esclarecimiento pero la posición del partido socialista

efectivamente sobre el irph creo que estamos de acuerdo estamos de acuerdo en que ha sido ya señalado reiteradamente que es una cláusula abusiva

usted dice que tratamos de eludir el debate le digo con franqueza no solo no tratamos de eludir el debate sino que además celebramos que se traiga este debate porque este es un asunto que

una gran incidencia social sobre la vida de las familias sobre las economías domesticas y por lo tanto es un tema que nos importa y que nos interesa no lo queremos eludir de ninguna manera

lo que pasa respondiendo un poco a la cuestión que usted planteaba en su intervención

por lo menos los socialistas cuando tratamos cuestiones de este carácter lo hacemos con una perspectiva global por las razones que sea

una particular misión que cumplir en esa entidad que viene señalando que no voy a poner en cuestión pero para nosotros los problemas son de los ciudadanos con independencia de cuál sea la entidad financiera con la que trabajan es decir

una iniciativa que plantea una oferta dirigida fundamentalmente a los clientes de kutxabank puede estar muy bien pero para nosotros el problema

ante todo un problema de alcance general al que trataremos de poner en la medida de lo posible nuestras aportaciones

no estamos en contra del debate no estamos tampoco en contra de los planteamientos generales que hace en su propuesta

le damos una dimensión de alcance más general como le digo por lo tanto asumida la responsabilidad de haber tenido una discrepancia y una falta de concordancia entre lo que plantea el partido socialista en las instituciones

y explicado el motivo pasamos a hablar de lo que realmente importa en este asunto por lo menos a juicio de nuestro grupo creo que

resulta un tanto ocioso creo que ha quedado acreditado por activa y por pasiva que son cláusulas abusivas y que forman parte de las prácticas bancarias que aquí y allá y en cualquier otro lugar

cargan y graban a las economías más domésticas

que vienen a crear grandes beneficios a las entidades financieras y esto es a lo que hay que poner freno y espero que estemos de acuerdo al menos en esta intención

se plantea hacerlo por el de euribor más uno punto que sería

más social de entender el indicador

de las hipotecas sin embargo me llama la atención que ustedes no hayan puesto de relieve un hecho que ha quedado también demostrado

se puede manipular y creo que ha quedado acreditado ha salido

que se han impuesto unas multas que aunque parezca millónaria en realidad es calderilla para lo que ganan las entidades financieras

que es el componente variable de los créditos hipotecarios porque el punto o las décimas de punto que plantee

la tasa anual equivalente en la que se incorporan comisiones gastos de gestión y demás

el tipo efectivo pero de todos estos componentes el tipo variable es el euribor y el euribor se puede manipular ha quedado acreditado

se puede llegar a plantear situaciones en las que un alza de ese tipo de interés pueda afectar a las cuotas de amortización de los créditos y provocar situaciones como seguramente han provocado con anterioridad esas cláusulas abusivas de las que hablamos por lo tanto nosotros venimos también ahora con una propuesta

le instamos al gobierno de españa en la transacción que hemos alcanzado con el partido nacionalista

agradezco su disposición para llevar adelante este planteamiento y es que efectivamente la referencia hipotecaría

pero qué ocurre si examinamos las evoluciones del euribor en los últimos quince años estos también pueden sufrir oscilaciones es decir la volatilidad del euribor

de tal naturaleza que la repercusión sobre las cuotas hipotecarias sea altísima por lo tanto nosotros lo que planteamos es que precisamente para lograr que esas cuotas se mantengan en una orquilla

estén obligatoriamente obligatoriamente salvo pacto expreso obviamente y solo para primera vivienda cubiertas con un seguro de tipo de interés

lo que pasa es que los instrumentos financieros hay que ponerlos al servicio de la economía de los ciudadanos

que en el futuro para evitar esas variaciones esos incrementos que pueden suponer las cuotas por

se lleve adelante una verdadera política social que consiste en que los instrumentos financieros estén al servicio

de prestamos o de créditos hipotecarios por lo tanto esa es la propuesta que hacemos que no es tampoco la panacea pero es la que permitiría en el futuro evitar por una parte cláusulas abusivas por otra parte evitaría alteraciones importantes sobre las cuotas de amortización de los créditos

un seguro de riesgo que permitiría efectivamente mayor tranquilidad mayor seguridad sobre los ciudadanos que suscriben todo esto señora beitialarrangoitia esa es la razón por la que nosotros traemos nuestra propuesta concreta

se refiere a todas las entidades y le insta al gobierno de españa efectivamente a que

esta situación para evitar en el futuro las cosas que han venido ocurriendo que han desembocado como muchas veces hemos podido ver en situaciones bastante dramáticas de desahucios y demás probablemente también como consecuencia de abdicaciones inapropiadas

egiten duzuena ez da hitz egiten duzuena hoy debatimos otro capítulo más de la historia de bildu y su ley del embudo

para bildu y la estrecha para los demás o lo que es lo mismo hagan lo que yo digo pero no lo que yo hago no predican con el ejemplo hemen ikurriña jarri

hori ez da cómo negar a otros los derechos que para nosotros reclamamos y el estado de derecho nos da cuando el propio partido la proponente y es probable que están gracias aquí a los recursos que hayan podido hacer es capaz no solo de usarlo sino incluso de llegar hasta el tribunal de justicia de la unión europea en luxemburgo

cómo negar el derecho a recurrir el que un juez señale al irph como manipulable un índice que está basado en el cómputo de prestamos reales

en el que todas las entidades bancarias se peleaban por adquirir los prestamos hipotecarios

o utilizaba otra referencia a continuación todas las entidades lo asumían era una pelea constante por quedarse con los prestamos hipotecarios eso hemos vivido

considerar que las cajas de ahorro puedan incurrir en prácticas conscientemente paralelas con otras entidades

legalidad en ningún momento las cajas han sido objeto de un procedimiento asociado a tal incumplimiento ante las autoridades de la competencia

creo personalmente que es mil veces más complicado manipular el irph que manipular un panel como el del euribor

no en prestamos reales es más la comisión europea ya ha multado a varios bancos por hacerlo en diciembre del año pasado la comisión europea ya multó

cómo negar el derecho a recurrir y poner en valor la disposición adicional quince de la ley catorce barra dos mil trece del veintisiete de diciembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

que el banco de españa deje de publicar lo que es este índice y se aplican los efectos desde la siguiente revisión se le pide también a las entidades bancarias que no tienen

y sino que el gobierno vasco suspenda sus relaciones económicas cuando las entidades solo cumplen la ley y aplican

esta suspensión de relaciones económicas con otras entidades financieras que utilizan el irph entidades y no el euribor en su quehacer diario en gipuzkoa no

con unas entidades bancarias que aplican los índices irph y el nuevo irph entidades

bankia un banco nacionalizado formado por siete cajas intervenida por el estado

recapitalización de bankia aprobado por la comisión europea deberá reducir la plantilla en un veintiocho por ciento

cuando ustedes firman ese prestamo ese es el fruto que tenemos que recoger del árbol de bankia que tiene el prestamo de cientos millónes con un interés más barato

o deberían ser otros los frutos más parecidos al mantenimiento del empleo de las industrias de la obra social en el territorio de gipuzkoa pero cómo no les van a dar un interés más barato una entidad con cinco mil doscientos trabajadores menos y que llegará a los seis mil en dos mil quince y con un rescate de europa de veintidós mil millónes de euros

como siempre la parte ancha del embudo para bildu y la estrecha para los demás hagan lo que yo digo pero no lo que yo hago lo dijimos el año pasado y lo vuelvo a decir hoy queremos que a todas las entidades bancarias se les aplique los mismos criterios

pero lo que tampoco vamos a pretender es que kutxabank o las cajas vascas sean siempre el pagano de todo kutxabank se enfrentó sin ayudas de estado al informe de las tres t

todas las entidades financieras tienen que hacer un esfuerzo sí

porque aquellas entidades bancarias que han sido rescatadas como con la que ustedes prestan y han

o que se niegan a aplicar estos nuevos índices por ejemplo parten con ventaja a la hora de realizar nuevas acciones y los que pagan las consecuencias y luego no son competitivas son siempre las mismas

kutxabank es un banco vasco con control vasco y con el centro de decisión en euskadi garantiza el apoyo a la industria a la economía vasca y al mantenimiento de la obra social la mayor de euskadi

en kutxabank se han ido sustituyendo estos índices por el euribor más uno de tal forma que a fecha de hoy están actualizados ya no vamos a meter ni a alaveses ni a vizcaínos porque tanto vital como bbk

solamente queda en kutxa y están actualizados al cien por ciento por mucho que el señor matute diga que no en kutxa el ochenta y cinco por ciento de todos los prestamos
están actualizados al euribor más uno y solo queda el quince por ciento mesedez isiltasuna por eso hemos pedido porque kutxabank

analizando caso por caso y eso es lo que le pedimos en el punto primero para ese quince por ciento que queda que siga analizando y en el punto dos

sí gracias presidenta este es un asunto que

hace prácticamente un año en concreto se debatió el asunto relacionado con los índices aplicables a los prestamos hipotecarios y de aquel debate

que si no recuerdo mal la inmensa mayoría de los grupos terminó apoyando y firmando y transaccional que visto lo visto evidentemente como suele pasar con otras tantas transaccionales que se apoyan y que se aprueban en este parlamento pues no sirvió básicamente para nada

lo habitual sobre todo cuando se trata de instar a determinadas entidades financieras o se trata de instar a kutxabank para que se comporte de una determinada manera no nos van a escuchar

defendiendo sus propios intereses en todo caso lo que se debería hacer desde aquí y también desde el congreso de los diputados es tratar de impulsar todas las reformas legales que sean necesarias para acabar con los abusos de la banca y con los abusos

creo que esto es lo que se debería hacer en lugar de instar permanentemente a determinadas entidades financieras o a kutxabank a comportarse de una determinada manera

en fin a partir de ahí como consecuencia de que se ha conocido una sentencia ciertamente interesante eh bildu presenta esta nueva iniciativa

es una sentencia la ciento cincuenta y seis barra catorce dictada por el juzgado de lo mercantil número uno de san sebastián consecuencia de la cual kutxabank debe devolverles a los afectados los intereses hipotecarios abusivos que les han sido cobrados recalculando todas las cuotas aplicando sustitutorio euribor más uno por ciento que era lo que tenía acordado el propio digamos denunciante los propios denunciantes en la hipoteca que tenía firmada y a partir de ahí eh bildu propone lo que propone algunas de las cosas que propone son irrealizables otras

cierta justicia pero que en todo caso nosotros no vamos a terminar

íbamos a votar nuestra enmienda aunque por razones distintas hemos decidido finalmente retirarla qué era lo que en nuestra enmienda

nosotros también proponíamos instar a kutxabank es cierto proponíamos instar a kutxabank a que aplique a la mayor brevedad posible las medidas recogidas en la sentencia como no podía ser de otra manera pero también es cierto y sabíamos

kutxabank no suele escuchar a este parlamento las entidades financieras no escuchan a este parlamento pero sí que es cierto que nosotros proponíamos instar a kutxabank

el contenido de esa sentencia y proponíamos también instar a todas las entidades financieras que operan en el país vasco a eliminar de sus prestamos hipotecarios cualquier variedad de irph y proponíamos también instar al gobierno de españa a garantizar la no aplicación en todas las entidades financieras del territorio nacional

de veintiocho de octubre de dos mil once y proponíamos instar al gobierno de españa a controlar el uso de otros índices que sin haber sido declarados abusivos

esto era lo que nosotros proponíamos finalmente hemos retirado la enmienda de totalidad porque sabíamos también que había un acuerdo amplio entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi para sacar adelante su propuesta en relación a la transaccional o en concreto

se quedan cortas y ciertamente me llama la atención que ninguna de ellas haga referencia

original en todo caso la enmienda del grupo socialista

el único índice de referencia hipotecaria y lo que proponía

instar a que se realice la inmediata sustitución

cajas bancos por el índice que en cada caso contemple el clausulado de los prestamos hipotecarios o por el tipo de interés de referencia seguramente propuestas

de ambas enmiendas nosotros nos vamos a abstener pensamos como digo que se queda corto en conclusión creo que el objetivo debería ser acabar con los índices bancarios abusivos como el irph abusar con los índices bancarios ilegales

acabar con todos aquellos índices bancarios que puedan incurrir en ciertas irregularidades aunque no hayan sido declarados abusivos o ilegales y que tanto

en los últimos tiempos creo que ese sería el objetivo fundamental y creo que para eso lo mejor no es tanto instar a determinadas entidades financieras a que hagan lo que nosotros pensamos que es justo

con los abusos bancarios acabar con las malas prácticas bancarias

los intereses generales de la ciudadanía creo que este sería el objetivo fundamental de este parlamento y de cualquier otro legislar legislar mejor
cambiar las leyes injustas para rescatar a los ciudadanos de tantas injusticias que han padecido en los últimos tiempos eskerrik asko maneiro jauna

muchas gracias señora presidenta bueno yo creo

no se ha eliminado ni porque fuera abusivo ni porque fuera ilegal y podía ser manipulable exactamente igual que como cualquier índice que se ponga

se ponga el de referencia obligatorio el euribor supongo que porque hoy es más barato que otros ahora si el euribor dentro de dos años es el doble de caro que otros entonces supongo que vendremos aquí a plantear que es que hay que modificarlo y cambiar otro bueno pues entonces a lo mejor lo que hay que dejar es que las cosas

pero bueno la sentencia del juzgado de lo mercantil

que por eso ustedes dicen que no se recurra porque saben que la efectividad que tiene es cero esa sentencia

ni siquiera va a ser obligatorio hacerlo ejecutarla antes del mes de noviembre y por lo tanto para el mes de noviembre todos los créditos hipotecarios estarán adaptados a la nueva ley por lo tanto

ni declara ilegal nada y por eso ustedes como lo saben pues dicen que no se recurra

en este debate que estamos teniendo hoy porque el debate hoy básicamente no es que las entidades financieras porque este problema no lo tienen las entidades financieras

y que afecta solo al quince por ciento pues afectará solo al quince por ciento pero lo que yo no entiendo es que si se hace una enmienda y me refiero al partido nacionalista vasco diciendo

para realizar la inmediata sustitución del irph es decir si el partido nacionalista vasco está porque aquí el debate es

el debate es que la ley lo que dice es que se sustituirá por los contratos pactados al vencimiento cuando toque renovar cada uno de ellos eso dice la ley

entonces yo cuando vi la enmienda del partido nacionalista vasco dije bueno pues nos parece muy bien en este caso kutxabank

ese cambio de índices porque se puede hacer no es obligatorio esperar como dice la ley a que

la renovación de tipos no es obligatorio entonces lo que no entiendo

permitir que no entiendo la transaccional a la que han firmado porque la transaccional que han firmado ya no se plantea esto que era teóricamente

la sustitución del tipo de interés en los créditos hipotecarios en un sitio muy determinado y resulta que

es imposible que vote en contra de que se cumpla la ley cuando además es una ley que la ha aprobado el partido popular en el congreso de los diputados cómo voy a votar en contra tengo que votar a favor de que se cumpla la ley

evidentemente pero aquí ya no se plantea la posibilidad de adelantar el cambio de tipos como lo planteaba el partido nacionalista vasco

desaparece eso que nosotros entendíamos que era lo positivo que se podía plantear y que kutxabank pues si el partido nacionalista vasco estaba dispuesto y de acuerdo a que se adelante en ese quince por ciento de contratos que quedan el cambio de cláusulas que se hiciera y luego yo el partido socialista hace una aportación en esta materia

la obligatoriedad de que cuando alguien vaya a contratar un prestamo además tenga que contratar un seguro

que evidentemente va a ser con la entidad bancaria de turno al precio que la entidad bancaria de turno ponga y como ponga porque estos de los seguros las hipotecas ya nos lo conocemos todos porque al final aquí ya no hay que mirar solo

cuánto se paga por el seguro entonces que obligatoriamente el partido socialista y que el partido nacionalista vasco acepte que obligatoriamente además hay que hacer

y de ahí a ponerlo obligatorio pues nosotros no podemos estar de acuerdo en que sea obligatorio

como no puede ser de otra manera cada uno verá

y por eso nosotros nos vamos a abstener en este punto segundo

y que el tipo sea el euribor pues será el euribor pondremos el euribor todos pues pongamos el euribor ahora cuando el euribor suba resulta que el euribor ya no era el bueno

yo creo que hay que ser un poco serios a la hora de coger y traer y plantear los temas y los asuntos

adelantaba o no la posibilidad de aplicar

a los contratos que todavía por ley en la mano hasta que no les toque

vista la transaccional que se ha hecho pues es evidente que parece que ha habido un cambio de postura por lo menos en el partido nacionalista vasco no sé si inducido por el pacto con el partido socialista no sé cuál de los dos

al uno o al otro a que no se haga el adelanto del cambio de los tipos de interés pero bueno como ya eso no se plantea sino que se plantea que se cumpla la ley
repito que nosotros como no puede ser de otra forma votaremos a favor de que se cumpla la ley eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz

no creo que porque hubiera un representante nombrado por el partido socialista porque si no lo hubiera

compartirá conmigo que por muchos exhortos que haya las entidades financieras harán lo que crean oportuno respecto del señor maneiro que nos hacía referencia a que no habíamos mencionado la sentencia no hemos mencionado la sentencia porque efectivamente

es un calvario para la gente tener que llevar adelante procedimientos judiciales con estos temas

las plataformas de afectados precisamente que llevan a cabo una labor importante

si pueden contribuir en alguna medida es para coadyuvar a que esas demandas puedan prosperar

al señor damborenea con toda humildad le digo porque yo ya sé que en ingeniería financiera ustedes están mucho más puestos que nosotros

pero claro lo que dice nuestra propuesta es obligatorio salvo pacto expreso eso en fin se entendería fácilmente diciendo que cuando

las entidades financieras debieran advertirle por defecto siempre de que la posibilidad

porque el euribor es el componente variable como he dicho antes y si miramos quince años atrás porque la vida de los prestamos suele ser de veinte veinticinco años vemos que

esto ha conocido tipos de hasta el cinco por ciento estas variaciones esta volatilidad

dar lugar a problemas como se ha vivido y entonces como usted bien dice

a quién reclamamos al maestro armero entonces las entidades financieras

obligatorio salvo pacto expreso es decir si alguien no quiere y

pero curiosamente las entidades financieras no los ofrecen

de manera que hubiera seguridad jurídica que hubiera garantías de que los ciudadanos cuando adquieren su primera vivienda bajo la modalidad de un prestamo hipotecario el rango de sus cuotas se va a mantener en una horquilla que va a ser asumible ocurra lo que ocurra y en el caso de que la volatilidad lleve adelante un incremento desmesurado de los tipos de interés que tendría una repercusión terrible

cubierto por un seguro de riesgo que son instrumentos que existen y que existen para los cambios de tipo de interés para los tipos de cambio los tipos de interés etcétera

que la innovación financiera puede permitir ahora que estamos además en una época de recesión esos instrumentos financieros tienen que estar precisamente dirigidos

por eso nos parece que una propuesta de esta naturaleza o similar serviría para que en el futuro porque usted lo ha reconocido y qué ocurre el euribor no se puede manipular ya lo creo ya lo hemos visto se puede manipular y mucho y qué ocurre si se vuelve a manipular cosa que a buen seguro ocurrirá porque es que en fin las inercias de unos y de otros siempre empujan y los bancos no se van a quedar ahora

y por lo tanto eso tendrá una incidencia y tienen entonces los ciudadanos que suscriben estos prestamos

los intereses porque ha habido una manipulación y tendrán que emprender luego acciones que no se sabe qué resultados tendrán porque claro esto se regula bajo la competencia pero en realidad alterar el precio de las cosas es un delito penal y sin embargo por estas cosas pues nadie paga verdad por eso creemos que

establecer instrumentos que permitan de una manera razonable evitar en un momento dado las familias y las personas que suscriben estos tipos de contratos

si alguien tiene que hacer un acto de fe de esta sociedad vasca de verdad es que con ustedes y a usted se lo puedo decir como miembro de sortu

heredera natural del mundo de batasuna en los últimos veinticinco años lo más cerca que ha estado el mundo de batasuna

y de un cajero automático ha sido precisamente de ellos pero para darles fuego ese es su historia y sus veinticinco años

de una caja vasca ha sido en el dos mil ocho esto es un trozo de lo que quedó

aquí en álava para la obra social y no contabilizo todo el histórico de sus veinticinco años la cantidad de dinero que tendríamos para obra social

de las cajas vascas con la sociedad vasca históricamente y desde hace muchísimos años le vuelvo a decir

lo que es kutxabank siempre ha estado trabajando con las familias y analizando caso por caso

que lo intente otra vez siempre está con las familias vascas se lo he dicho que en álava no queda nada en bizkaia no queda nada qué ocurría que en gipuzkoa

han utilizado en gipuzkoa el irph por qué

nadie quería perder el mercado qué ocurre que en kutxabank sí que tienen el índice sustitutorio

y ya lo está haciendo y solo quedan el quince por ciento pero el resto de entidades financieras entre las cuales está bankia y las españolas con las que ustedes han contratado ese prestamo siguen utilizando el irph de entidades que los clientes no van a notar casi nada de la diferencia pero los que estén en kutxa sí

o el japonés o el americano al final habrá que coger uno y fiscalizarlo bien porque ya le digo

sabemos que el día a día es muy complicado pero hay que hacerlo

en el día a día por construir este país nos tendrán juntos pero no coja la solución fácil que es la de destruir dividir

que nos intervengan el estado después que se la vendan a una caja y acabemos en bankia

eso no es el futuro para kutxabank eskerrik asko eskerrik asko carro jauna mistoa

señor itxaso yo no sé si soy más experto financiero que usted pero sé leer lo que usted nos ha planteado y usted no nos ha dicho que ese seguro obligatorio

eso no viene en su propuesta en su propuesta lo que dice es que se aplique el euribor salvo pacto expreso en contrario y con la obligatoriedad de incorporar un seguro es decir puede que no se aplique el euribor en un pacto es lo que ustedes plantean pero obligatoriamente haya que hacer otro seguro de los que ya obligatoriamente te exige cada una de las entidades financieras cuando vas a contratar

y usted nos plantea la obligatoriedad de otros seguro que evidentemente va a ser la entidad financiera la que nos diga además cuánto nos va a costar

el coste ese al tipo de interés que me van a cobrar por la hipoteca y a lo mejor resulta que me está saliendo aquí la broma peor de lo que era y señor carro no se me ponga no se

que nosotros íbamos a votar a favor de su propuesta de que kutxa y las demás entidades adelanten adelanten sin esperar que se vaya cumpliendo lo que obligatoriamente

porque se puede adelantar a que adelante el cambio de los tipos de interés en este caso en gipuzkoa a los pocos que faltan según usted y que les aplique el euribor más uno

eso desaparece desaparece de su transaccional

lo que dice la ley que yo evidentemente le digo que estoy de acuerdo con lo que dice la ley pero también estaba de acuerdo con ustedes en que se podía adelantar el cumplimiento de la ley

no nos los plantean y ya por último y para terminar no se ponga nervioso

es evidente que son coherentes trabajando con bankia en gipuzkoa porque es el único banco público

posible dela frogatua dago arduragabekeria hutsa izango litzateke ez aprobetxatzea señorías el dieciséis de mayo de dos mil trece este parlamento todas las fuerzas políticas de este parlamento con excepción de eh bildu

una proposición no de ley para dar impulso al trilingüismo en los centros educativos de la comunidad autónoma vasca hoy damos un paso más un paso muy significativo porque lo que pedimos la mayoría de esta cámara es que el parlamento vasco

a implantar de forma progresiva y con carácter general la educación trilingüe a generalizar la educación trilingüe progresivamente naturalmente con una atención preferente al euskera para que todo

con competencia real en euskera y en castellano y una competencia suficiente en la tercera lengua en la lengua extranjera siempre en un marco

en coherencia pedimos también que se adopten las medidas para reforzar la capacitación lingüística y metodológica de los docentes esto es cumplimiento además de los objetivos de la unión europea para dos mil veinte veinte como ustedes conocen en dos mil diez

en marcha un plan piloto de experimentación llamado marco de educación trilingüe con dos instancias

con una muestra tremendamente representativa muy representativa tanto por su distribución territorial como por redes educativas y por los estratos sociales del alumnado nos interesó mucho

en el diseño del proceso se atendió sobre todo con especial cuidado al seguimiento y apoyo a los centros a la formación metodológica del profesorado de los centros

conocen señorías se ha realizado con la dirección del instituto vasco de evaluación y con la colaboración de dos prestigiosas instituciones internacionales

como no podía ser de otra manera para una experimentación que iba genuinamente a conocer la verdad se trataba por decirlo de forma resumida y si esto no hubiera sido conseguido habría que haber buscado otras herramientas de producir

sin que esto y esta era una condición sine qua non supusiera ningún freno

en las competencias lingüísticas en euskera supuesto en castellano ni tampoco en la adquisición de conocimientos en las materias que se impartieran en inglés era una cuestión capital condición sine qua non

los objetivos de este proceso experimentación eran los siguientes con toda claridad producir un rendimiento similar entre los que estaban en el plan de experimentación

de control en las lenguas uno y dos lengua materna y

la segunda lengua oficial este rendimiento similar se ha producido no ha habido ningún deterioro

evaluadas durante el proceso en este caso la competencia matemática y la competencia científica era similar y se ha producido es similar es similar en algún caso incluso mejor en la competencia científica

similar tercer punto si el rendimiento en inglés

era significativamente mayor en los grupos sujetos al plan piloto que en el resto una cuestión que también se ha producido

presentó en la comisión de educación del parlamento vasco los datos de la evaluación

los resultados en inglés señorías son espectaculares los datos y esto es científico son datos no son opiniones que en solo tres años por lo tanto esto habrá que extrapolarlo también a otras cosas que nos interesa conseguir

obligatoria acogido al marco de educación trilingüe obtiene niveles altos o muy altos de inglés obtiene

o be dos por hablar del marco de referencia del aprendizaje de las lenguas europeas y triplica de esta manera

los resultados que son inferiores al veinte por ciento de los alumnos que no participaron en la experiencia piloto se confirma así

no hasta el infinito es decir si todo lo pusiéramos en inglés habría un momento en que no se podría aprender ya más inglés es decir no hasta el infinito

por tanto esto también tiene consecuencias digo se confirma que el mayor contacto con la lengua hasta un umbral un mínimo del veinte por ciento del tiempo curricular o su equivalente en asignaturas es decir la asignatura de la lengua extranjera más

mejora notablemente los resultados en su aprendizaje

a de ser no solo objeto de enseñanza así enseñaban antes y no se aprendía nada como asignatura si no sobre todo instrumento para el aprendizaje de otras materias y se confirma además

en el dominio del inglés no han supuesto ningún freno en la progresión de las competencias lingüísticas de euskera y castellano ni en aquellas materias

a la par que los grupos de control no participantes en esta experiencia por tanto hay una transferencia de contenidos de aprendizaje que es igual y esto es una cuestión que no se discute ya entre los filólogos

porque miren ustedes nosotros no nos podemos mantener aislados vivimos en un mundo globalizado en un mundo internacionalizado

es decir hay cientos de millónes de personas en países emergentes que están sirviéndose de los buenos resultados de la globalización por tanto nuestros jóvenes tienen que gobernar ese mundo globalizado y tienen que estar perfectamente preparados para hacerlo el inglés

de europa y del mundo internacionalizado

que se acoja y que se asuma como una herramienta elemental de trabajo al igual que las tecnologías de la información es preciso sobre todo en un país

a ocupar un lugar puntero en el panorama europeo internacional por eso la necesidad de extender el trilingüísmo a la enseñanza vasca

pero debe estar sostenido en una escuela que tiene entre sus funciones la de mitigar las desigualdades en una escuela bilingüe

en un espacio democrático con una política lingüística democrática y con la atención preferente al euskera es el que debe acoger además el inglés u otra lengua extranjera como primera determinación en segundo lugar por tanto esta lengua extranjera ha de ir a todos los centros educativos estén donde estén

y esto ha de hacerse también con cuidado también con consideración

de objetivos concreta y clara concreta y clara como somos bilingües propongo que los hasta cuarto curso de primaria nos dedicamos sobre todo al bilingüismo

y hasta cuarto curso de secundaria fijemos también la lengua extranjera

con una competencia real en euskera castellano y desde luego con competencia suficiente en la lengua extranjera señorías es el momento de hacerlo todo el mundo se mueve en dirección a aprender

a aprender a adquirir lenguas extranjeras tenemos centros educativos en la comunidad que están trabajando ya en cuatro lenguas y desde luego no podemos dejar de movernos en la generalización de al menos el conocimiento

por tanto fijación concreción de objetivos nosotros propondríamos que para el dos mil diecinueve dos mil veinte

hasta cuarto de enseñanza secundaria la formación del profesorado es capital nuestro modelo no es importar profesorado de fuera nuestro modelo es trabajar con el profesorado de dentro

suficiente pero hay que continuar con el trabajo de formación de manera muy clara y de manera muy determinante por todo ello señorías yo en fin hemos

esta proposición no de ley hoy cuyo paso es implantar progresivamente y con carácter general el trilingüismo viene respaldada

por tres grupos parlamentarios upyd no tenía enmienda por el partido popular partido nacionalista vasco

y en estos treinta segundos aspiro también a que bildu se una a esta proposición no de ley porque tiene razones suficientes

de su gobierno era que se impulsara el inglés eta gaur celaá andreak bere diskurtsoak hori behin

non eta zatozten gaur erdibidetzera y paso muy significativo en qué señora celaá porque esto no es más que una declaración de intenciones lo que ustedes han firmado aquí es una declaración de intenciones cuando ustedes en su propuesta original estaban planteando

podemos estar de acuerdo y podíamos empezar a hablar cuando estos señores señoras señora defendía totalmente lo contrario que hay que seguir con los modelos lingüísticos por lo tanto no sé cómo

tan distantes pueden encontrar lo que ustedes hoy han encontrado pero en definitiva

partidu popularrekook eta partidu sozialistakook la atención preferente al euskera

atención preferente hori batetik que el alumnado sea capaz

como el que vivimos hoy en españa sí que quiero hacer mención a que la mayoría de los vascos la inmensa mayoría de los vascos señora presidenta nos sentimos representados hoy nos hemos sentido representados hoy en las cortes generales por nuestros representantes

vascos en las cortes generales estaban hoy acompañando al rey en su proclamación y hoy como vasco y como español también me quiero sentir orgulloso

y en honor también a nuestra historia a nuestra historia como vascos a la historia de los alaveses de los vizcaínos y de los guipuzcoanos

nuestro compromiso con el proyecto común de españa benga con el compromiso nuestro compromiso con la corona

hoy en nombre de muchos vascos que hoy quieren celebrar este día lo hago hoy expreso en esta tribuna y paso a referirme a la cuestión y

señora celaá es la defensa del trilingüismo y especialmente también hoy porque en su primer discurso

felipe sexto ha hecho mención a la defensa ha puesto en valor la defensa de la lengua vasca y del resto de las lenguas de españa hoy exactamente porque nos trae aquí la defensa de nuestras lenguas de las lenguas oficiales

de un proyecto de oportunidad y futuro para defender una educación trilingüe

en un día en el que también el rey se ha querido despedir agradeciendo al conjunto de los españoles también en nuestra lengua en euskera

yo quiero salir a reiterar nuestro apoyo

en nuestro sistema educativo en nuestra escuela a la necesidad que tenemos de apostar por nuestras lenguas y dar una oportunidad

a las próximas generaciones la oportunidad que no tuvimos que no tuvieron otras generaciones en nuestra comunidad de tratar de formarse

y en inglés con una atención preferente a la lengua vasca porque efectivamente es una lengua a la que tenemos que apoyar pero tenemos que apoyarla como siempre hemos dicho nosotros

de los jóvenes de la ciudadanía vasca sin imposiciones y por eso con las experiencias que tenemos ya las experiencias de trilingües a lo largo de esos programas que puso en marcha

tenemos elementos suficientes que nos pueden llevar a la convicción de que es posible trasladar al conjunto del sistema educativo en euskadi

con especial atención a la escuela vasca para que no se quede atrás para que no pierda oportunidades oportunidades que están ganando ya

que hoy quieren que sus hijos terminen la etapa obligatoria con un conocimiento suficiente en las tres lenguas el euskera el castellano y el inglés y que es una oportunidad que no debemos desaprovechar en este momento que debemos impulsar y que además es un valor que va a fortalecer también a la escuela pública en euskadi queremos de verdad instar desde aquí con nuestra firma en esta transacción al pnv y al gobierno vasco

equilibrado flexible pero equilibrado que sea respetuoso también

con nuestras lenguas oficiales pero que sea de verdad un modelo que sea valiente

a aceptar también los nuevos retos de futuro para que los jóvenes vascos puedan competir

también y que tengan las mejores herramientas en su vida para afrontar el mercado laboral no quiero entrar en ningún debate con quienes han abandonado la sala no tendría ningún sentido no tiene ningún sentido que hoy discutamos creo que hoy es el día para que

la defensa de las lenguas en la educación la defensa

también en la educación pero sobre todo la apuesta por una educación por una educación trilingüe creo que nos quedamos con el acuerdo alcanzado con el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos para que de verdad el gobierno se atreva a impulsar sin miedo y sin ningún complejo este proyecto

eztabaida hura baino askoz lehenagotik datorren jarrera casi creo que podría resumir nuestra posición en cuatro preguntas

el pnv está a favor del plurilingüismo por supuesto el pnv apuesta claramente por el plurilingüismo el pnv está a favor de extender

se llame como se llame a la totalidad del sistema educativo no no está a favor de marcos únicos por qué porque no creemos en planteamientos de pensamiento único el pnv cree que la normativa vigente tiene margen para seguir avanzando en el tratamiento de las lenguas sí está convencido de ello

el euskera debe ser una lengua de atención preferente el eje debido a la situación de desigualdad y desequilibrio que vive en nuestra sociedad por supuesto que sí

tiene un objetivo claro impulsar una enseñanza moderna abierta al mundo y plurilingüe que permita desarrollar nuestra identidad así como la universalidad y que refleje la imagen de un país multilingüe de base bilingüe

apostamos por lo que recogíamos en nuestra enmienda de totalidad apostamos por seguir impulsando una educación plurilingüe

con el euskera como eje central dentro del sistema de modelo lingüísticos vigente en cada momento y respetando siempre la autonomía de los centros y la voluntad de las familias con el objetivo de que el alumnado alcance con carácter general una competencia comunicativa avanzada en euskera y castellano y suficiente en inglés al finalizar la educación obligatoria sin excluir la posibilidad de adquirir conocimientos básicos de una cuarta lengua siempre y cuando los centros lo tengan previsto proyecto lingüístico defendemos un sistema plurilingüe para nuestra red educativa pero no estamos de acuerdo con cualquier sistema educativo presuntamente

valoramos positivamente las experiencias que diversos centros educativos vienen desarrollando las últimas décadas y consideramos que hay que extraer las mejores prácticas de todas esas experiencias acumuladas

kontu batean behintzat bat datozela visto lo visto parece que lo que persigue más de un grupo es la superación del sistema de modelos lingüísticos que nos han permitido y dado garantías para llegar hasta aquí la oposición común no solo reside en el interés por superar el sistema sino que también coincide en que pretende implantar un único modelo cada uno eso sí el suyo hay quien pretende romper el consenso político y social además de saltarse la normativa vigente

esté donde esté y sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia hay quien muestra interés por extender un modelo trilingüe único un marco que vendría ser la generalización de un submodelo del actual modelo b

ni el de un extremo ni el del otro por qué porque no creemos en planteamientos de pensamiento único creemos en la diversidad sabemos que una buena gestión de la diferencia no hace más que enriquecernos

en dar autonomía a los centros para que tomen decisiones para que desarrollen sus propios proyectos lingüísticos

en la evaluación pero que han de ser claves a la hora de abordar cualquier propuesta de mejora de los modelos lingüísticos vigentes e ir avanzando hacia el plurilingüismo mientras la correlación entre el número de horas de currículum

es manifiesta en el caso del castellano la correlación es dudosa o inexistente por tanto a la hora de hacer una distribución horaria habrá que tener en cuenta

no se pueden tratar todas las lenguas al mismo nivel y con los mismos condicionantes consideramos fundamental que cada lengua cuente con las horas de exposición y trabaja que necesite estableciendo objetivos lingüísticos concretos

sí gracias presidenta yo quiero decir que lo más importante no es tanto lo que diga el nuevo rey felipe sexto

sobre todo lo más importante es lo que seamos capaces de hacer los partidos políticos democráticos para llevar adelante todas las reformas que el conjunto del país necesita creo que esto es lo más importante que seamos capaces entre todos en este nuevo tiempo

de luchar más y mejor contra la corrupción política de mejorar la imagen de las instituciones de ganar en transparencia de acercar la política a los ciudadanos

y también de dar pasos importantes para reformar profundamente la constitución española esto es realmente importante por lo tanto más allá de discursos lo que seamos capaces de hacer los partidos políticos para llevar acabo

y nosotros evidentemente esperamos que el nuevo rey acompañe en la consecución de todos estos asuntos que son de extraordinaria importancia

quiero decir que estábamos básicamente de acuerdo con la iniciativa original planteada por el grupo socialista y con los argumentos expuestos en esta justificaciónde la iniciativa original del grupo socialista

del grupo socialista y que incluso estábamos muy de acuerdo con la transaccional que inicialmente iban a firmar el partido socialista

popular otra cosa es evidentemente qué es lo que finalmente han terminado firmando con el partido nacionalista vasco y evidentemente yo pediré explicaciones al conjunto de los grupos para que se nos aclare efectivamente qué es lo que se propone en esa transaccional y si los tres grupos están básicamente de acuerdo

el grupo digamos nacionalistas vascos ha sido más explicito en relación a qué es exactamente lo que defiende el grupo socialista también pero quizás algo menos y el grupo popular digamos que no ha concretado que es exactamente o qué modelo lingüístico o qué formula lingüística o qué política lingüística defiende el conjunto de euskadi en lo que se refiere a upyd tengo que decir que siempre hemos apoyado la implantación del modelo trilingüe cosa que este gobierno

más favorable en priorizar el euskera como dejaba claro la enmienda de totalidad del grupo nacionalistas vascos cuando decía

y como por otro lado ha venido dejando claro la consejera en sus distintas comparecencias

no es la solución y creo que lo que básicamente les preocupa son dos cosas por un lado que la introducción del inglés podría ser a costa del euskera y que no hay suficientes profesores formados en inglés en esto último tiene

una implantación de la educación trilingüe de forma progresiva

progresiva con el indispensable reforzamiento de la capacitación lingüística en inglés de los profesores cosa que obviamente requiere de compromisos presupuestarios

exitosa la experiencia piloto demuestra que se mejora en inglés y no repercute negativamente en el euskera ni en castellano

del inglés como lengua para impartir materias no merma las competencias en euskera ni el aprendizaje de contenidos como matemáticas o ciencias ha sido por tanto

iniciada por el anterior gobierno socialista ha demostrado que mejora el aprendizaje del inglés y no afecta al nivel de euskera y castellano ni a los conocimientos que adquiere el alumnado creo que lo ha explicado de manera pormenorizada la portavoz

por eso parecía razonable la propuesta del grupo socialista y la enmienda del grupo popular y la transaccional que inicialmente iban a firmar para que se vaya generalizando

vasco después tenemos lo que tenemos que es la transaccional firmada con el partido nacionalista vasco más allá de que lo más importante son los contenidos

habrá que volver a insistir en la extraordinaria importancia que tiene el inglés por una sencilla razón porque es la lengua más importante del mundo porque es la que más se habla porque gracias al inglés podemos comunicarnos con un mayor número de personas por eso son importantes las lenguas

te permiten hablar y comunicarte con más hablantes los más importantes son el castellano y el inglés junto con el chino el castellano ya lo tenemos porque es lengua propia de los vascos junto con el euskera ahora se trata de manteniendo y perfeccionando lo que ya tenemos aprender más y mejor el inglés

en el futuro el inglés tiene una extraordinaria importancia en el mundo laboral

te permite acceder a contenidos a los que de otro modo no accederías facilita viajar y conocer mejor el mundo que nos rodea tiene una extraordinaria importancia en la economía es la lengua en la que se desarrollan la mayor parte de las relaciones internacionales es un idioma en el mundo globalizado en el que vivimos esto es lo verdaderamente importante los nacionalistas deben abandonar su cortedad de miras

y sus miedos cosas que le hacen tener miedo y dudar

porque nuestros niños y nuestros jóvenes lo necesitan porque sería extraordinario para ellos ser competentes también en inglés en fin por todo lo que he señalado

quiero pensar que esta transaccional significa que realmente este gobierno apuesta decididamente por la implantación progresiva y con carácter general

pero lo cierto es que ahí se incluye determinada frase concretamente se dice que con una atención preferente al euskera y esto junto con el discurso del grupo nacionalistas vascos lógicamente me hace en relación a qué es exactamente lo que se está proponiendo no sabemos bien lo que significa esto de con una atención preferente al euskera ni qué puede llegar a implicar ni qué se pretende con ello tienen la misma propuesta lingüística

el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco yo pediría que se me responda para saber si en los últimos tiempos ustedes

este nuevo modelo o esta nueva política lingüística queremos saber qué es exactamente lo que se propone y qué implicaciones tiene la firma de esta qué es lo que propone cada grupo y si los tres grupos que han firmado esta transaccional están básicamente de acuerdo en lo que han firmado porque ciertamente algunos grupos han resaltado más algunas partes de esta transaccional otros han otras y otros no han resaltado ninguna y algún grupo ha hecho su propio discurso digamos en paralelo a lo que finalmente se ha firmado en esta transaccional

que debe garantizarse que el castellano vaya a seguir siendo lengua vehicular que se debe respetar el derecho a estudiar y obviamente también en euskera y que hay que hacer los esfuerzos presupuestarios necesarios para que los profesores tengan día a día una mayor capacitación lingüística

y a la introducción del inglés sí a la capacitación idiomática de los profesores sí a que se garantice en todo caso que cualquiera de nuestras dos lenguas euskera y castellano

en la enseñanza sí a que el alumno logre al finalizar la etapa obligatoria una capacitación suficiente en las dos lenguas oficiales y también en inglés

lingüística yo no sé si estos principios los comparten el resto de grupos todos los grupos o solamente algunos de los grupos pero en todo caso

mejor qué es lo que ustedes han firmado en qué están de acuerdo y en qué no y finalmente decidiríamos nuestro voto gracias eskerrik asko